eta hazkunde jasangarria hau da eusko jaurlaritzaren norabidea nuestro norte es una estrategia de desarrollo humano e integrador que sitúa el compromiso con las personas en el frontispicio de la acción de gobierno salud educación políticas sociales igualdad cultura

la modernización de las infraestructuras la internacionalización el apoyo a los sectores económicos y a las pequeñas y medianas empresas crecimiento

sobre la base de la innovación la especialización económica el desarrollo tecnológico y la investigación básica de excelencia una estrategia sostenible desde el punto de vista financiero y medioambiental esta es la estrategia para todos los departamentos

a continuación un resumen de sus principales iniciativas en el marco del programa de gobierno

valores imprescindibles para el buen funcionamiento de la administración y generar confianza en la ciudadanía en una experiencia inédita en nuestro entorno

en respuesta a las consultas planteadas por las y los altos cargos del gobierno y a las denuncias presentadas por terceros todas ellas están publicadas en la web

el gobierno vasco es una administración avalada al máximo nivel por transparencia internacional

antes de finalizar el año remitiremos a este parlamento el proyecto de ley de transparencia y participación ciudadana así como el de organización y funcionamiento del sector público vasco ambos textos están redactados tomando en consideración las aportaciones de los grupos de la cámara

el proyecto fue remitido a la cámara hace un año y ha entrado en la última fase de tramitación el objetivo es reforzar el municipalismo vasco dotándolo del máximo nivel de autonomía y solidez institucional la ley municipal incluye la creación del consejo vasco de políticas públicas este foro es una oportunidad para articular los servicios públicos clarificar las competencias concertar las políticas

hemos remitido al parlamento la ley de ordenación del servicio jurídico y la ley de fundaciones en unos meses remitiremos el proyecto de ley de empleo público una vez el nuevo consejo de la función pública emita su informe en el marco del plan de innovación pública el modelo aurrerabide de gestión avanzada

este año suscribiremos con las diputaciones forales los convenios de interoperabilidad para compartir las bases de datos

en justicia nuestro compromiso es avanzar en la modernización y eficiencia de este servicio público en euskadi

de vitoria gasteiz y barakaldo el próximo paso será la oficina judicial de donostia san sebastián en relación a la asistencia jurídica gratuita

y mejorar el servicio para que las personas que carecen de recursos

destaco el impulso de la justicia restaurativa y el fomento del derecho colaborativo el plan de justicia juvenil que acabamos de aprobar

y su éxito se basará en la función educadora seguimos también implicados en las políticas de gobierno abierto a través de irekia

la participación y el codiseño de las políticas públicas como muestra de este compromiso irekia en participación y emakunde en igualdad han recibido este año sendos reconocimiento de naciones unidas

todos los indicadores económicos eran de signo negativo

el segundo trimestre de este año el producto interior bruto ha crecido el dos coma siete por ciento el índice de producción industrial el tres coma dos por ciento

la tendencia es de crecimiento moderado pero crecimiento somos prudentes asumimos

nuestra apuesta es la digitalización de la industria el proyecto

apostamos por la especialización en los sectores de energía fabricación avanzada y biociencia salud

con prioridades en europa estados unidos y países emergentes mantenemos el apoyo a la estrategia de internacionalización de las empresas

el programa global lehian ha atendido trescientos cincuenta y siete acciones apoyamos siete nuevas implantaciones productivas en el exterior hemos favorecido cuatrocientos iniciativas de asociaciones sectoriales

cuatrocientos empresas han participado en las veinte misiones comerciales con las cámaras de comercio hemos apoyado quinientos diagnósticos y planes de diversificación de destinos comerciales estos datos

para atraer inversión extranjera y estos son los resultados

cinco empresas con cuarenta y nueve millónes de inversión cuatrocientos ochenta puestos de trabajo creados o mantenidos el año dos mil quince en lo que llevamos de año dos mil quince son ya diez nuevas iniciativas aseguradas una inversión de ochenta y siete millónes y setecientos veinte puestos de trabajo

vascas vamos a reforzar la red exterior de spri y crear dos nuevos programas de apoyo a la internacionalización

la tecnología esuna apuesta de país y vamos a poner en marcha la nueva agenda digital euskadi veinte veinte estamos generando futuro económico

administración empresa y agentes sociales tenemos el reto de facilitar la inserción de la juventud y las personas mayores de cuarenta y cinco años un ejemplo de referencia son los planes locales y comarcales de empleo

para impulsar el emprendimiento y apoyar la creación de nuevas empresas en relación a la política pública de vivienda comienzo por destacar

de la ley de vivienda su puesta en marcha podría estar condicionada por la decisión que adopte el gobierno español sobre la presentación de un recurso de inconstitucionalidad

de las políticas necesarias para nuestro país el gobierno vasco está adecuando su política a las nuevas determinaciones de la ley además impulsamos los dos ejes estratégicos del plan director facilitar el acceso a la vivienda en régimen de alquiler

priorizando mejoras de accesibilidad y eficiencia energética ejemplos de estas actuaciones

o el proyecto de rehabilitación integral del barrio coronación de vitoria gasteiz que acaba de confirmar la unión europea

euskadi es una de las sociedades más envejecidas de nuestro entorno y tiene un serio problema en la tasa de reposición poblacional nuestro compromiso es

una nueva estrategia de apoyo a las familias e inversión en la infancia compartimos la necesidad de impulsar medidas que permitan a las familias tener las y los hijos que deseen que no tengan que limitarse a los que pueden condicionadas por su situación económica

el rigor económico y la mejora de la eficiencia en la administración han sido dos principios de trabajo de este gobierno que inició la legislatura con la reducción de su propia estructura

seguimos dando pasos en la aproximación de un sector público más

la nueva realidad institucional nos ofrece una oportunidad de abordar el redimensionamiento público desde criterios de colaboración reconozco

y mejorando estamos comprometidos con las políticas de consolidación fiscal y control disciplinado del déficit hemos logrado estabilidad económica

hemos alcanzado un acuerdo con las entidades financieras para responder a las necesidades de financiación de las empresas se han logrado acuerdos con las diputaciones forales para desarrollar actuaciones de reactivación económica y proyectos de inversión

se ha promovido en euskadi una reforma de carácter integral hemos alcanzado un acuerdo con el gobierno español para incorporar al sistema del concierto los nuevos impuestos

hemos acordado los límites de déficit hasta dos mil diecisiete y el gobierno vasco mantiene el objetivo de consolidación fiscal en el horizonte de poder alcanzar un escenario de estabilidad presupuestaria en dos mil dieciocho no es suficiente tenemos que seguir optimizando nuestros recursos

incipiente y está sujeta a riesgos sabemos que venimos de una crisis profunda en la que no todas las necesidades no todas las necesidades han podido ser

el rigor en la gestión y la asignación de prioridades es esencial vamos a seguir trabajando para mantener los servicios públicos las políticas sociales y los proyectos de recuperación económica esto es

desde el realismo destaco el esfuerzo legislativo del gobierno para asentar los pilares económico financieros con normas como la ley del plan vasco de estadística

remitido a esta cámara la regulación del régimen subvencional de la comunidad autónoma proyecto de ley que aprobaremos en unos meses me centro a continuación en la educación servicio público esencial y garantía de una sociedad con capacidades y futuro nuestras señas de identidad son el consenso la estabilidad y la equidad la búsqueda del acuerdo y la defensa del autogobierno

de procesos de participación así estamos avanzando en el desarrollo del plan heziberri dos mil veinte

en que el alumnado adquiera las competencias necesarias para la vida aprender a ser convivir comunicar o tener iniciativa además de adquirir competencias como la científica tecnológica lingüística matemática social artística o motriz

por primera vez todos los agentes educativos sociales y políticos han tenido la posibilidad de participar en la elaboración de un decreto curricular que es competencia del gobierno vasco este es el punto de partida para iniciar los trabajos que desemboquen

en el ámbito de la formación profesional euskadi cuenta con una larga tradición de cambio y adaptación a las necesidades de las empresas destaco las siguientes realizaciones

impulso a la formación profesional dual y puesta en marcha de programas individualizados para cada empresa proyectos de innovación aplicada con las pequeñas y medianas empresas

creación este curso de ochenta y cinco empresas a través de los centros de formación profesional proyectos de internacionalización con veinticinco países y colaboración con el programa lehen aukera este desarrollo de la formación profesional se ve reforzado con la apuesta por la educación superior y la investigación universitaria impulsamos el papel propio de la universidad en la mejora investigadora científica y tecnológica hemos aprobado el plan universitario apostamos por la recuperación y atracción de talento

para quienes se sientan atraídos por nuestros centros de investigación y polos de conocimiento apoyamos la capacidad investigadora del país a través de la labor estratégica de la fundación ikerbasque y la red de centros berc

la igualdad de oportunidades de uso de las dos lenguas oficiales

avanzamos gracias a la implicación y la actitud de la ciudadanía favorable al euskera el compromiso de los poderes públicos la utilización del autogobierno a favor del euskera

el esfuerzo de muchas personas la actitud de miles y miles de euskaldun berris todo esto ha situado al euskera en la vía de crecimiento

es necesario que ese crecimiento sostenido sea sostenible vamos a seguir avanzando hacia una mayor igualdad lingüística y una mejor convivencia

delitu eta falten tasak jaisten ari dira euskadi es hoy un país razonablemente seguro las tasas de delitos y faltas están bajando

su presencia es una evidencia con más de doscientos patrullas simultáneas

una red de veinticinco comisarías más de cuarenta puntos de atención ciudadana

permanente de patrullas de tráfico reconozco que en seguridad vial tendremos que fortalecer nuestras políticas la concienciación social y la colaboración interinstitucional esta legislatura hemos emprendido el desarrollo de un nuevo modelo policial en la ertzaintza que recupera su espíritu fundacional

de la amenaza terrorista de eta y dirigido a la renovación constante de la inteligencia policial hemos apostado por modernizar la organización aligerar su estructura y aplicar una gestión basada en eficacia y eficiencia

la pasada semana se incorporaron los ciento veintiuno alumnos y alumnas de la vigesimocuarta promoción

contra la convocatoria de la vigesimoquinta promoción vamos a seguir trabajando para incorporar a la academia de arkaute las doscientos cincuenta personas ya seleccionadas antes de que finalice el año anuncio que en dos mil dieciséis convocaremos una nueva promoción para garantizar el mantenimiento de una ertzaintza

es inadmisible que el gobierno de españa intente limitar la capacidad de incorporar nuevos agentes

por otro lado hemos puesto en marcha el plan de seguridad preventiva ante la amenaza del islamismo radical en europa lo hacemos en estrecha colaboración

preocupadas también ante esta situación seguimos mejorando la colaboración con ayuntamientos servicios de extinción de incendios grupos de protección civil y organismos relacionados con la seguridad pública y privada esta colaboración se da con el resto de fuerzas de seguridad

con las policías locales insisto en la necesidad del trabajo conjunto en el ámbito judicial o con el ámbito judicial y el resto de órganos policiales vamos a seguir reclamando una mayor participación directa en los ámbitos de coordinación policial internacional quiero referirme a la violencia doméstica y de género es una prioridad

es un foco de violencia inaceptable que debemos combatir fomentando la igualdad a través de las políticas de emakunde

la expresión más brutal de la desigualdad necesita una respuesta multidimensional trabajar sobre los efectos de la violencia contra las mujeres y sobre sus causas trabajamos para superar el problema estructural de la desigualdad

tengan los mismos derechos las políticas de igualdad coordinadas por emakunde inciden en todos los ámbitos educación salud

seguridad o urbanismo un ejemplo de referencia es el trabajo con el sector

para establecer un código deontológico y autorregulación

este es un servicio público y universal prioritario para el gobierno vasco euskadi es la comunidad que más invierte en este servicio

de la media europea dinero bien invertido porque euskadi se ha situado por primera vez como la comunidad que mejores servicios sanitarios ofrece a la ciudadanía

hemos puesta en marcha el plan de salud dos mil veinte aprobado y evaluado por este parlamento

cáncer colorrectal o metabolopatías también proyectos de prevención en relación a menores y consumo de alcohol o el proyecto de ley de adicciones

más completos y modernos de europa la última incorporación ha sido la vacuna del neumococo el pasado uno de julio seguimos mejorando los equipamientos en los últimos doce meses se han desarrollado inversiones en los centros de salud de mungia alonsotegi y zestoa unidades de resonancia magnética de zumarraga y donostia

edificio de consultas externas de goierri alto urola o área de observación de urgencias de bidasoa

el gobierno es consciente de los retos que afrontamos para mantener la calidad de este servicio por el progresivo envejecimiento de la población asociado al incremento de la prevalencia de las enfermedades crónicas

osakidetza se prepara integrando los servicios de atención primaria con los hospitalarios

osi además trabaja de manera más coordinada con los servicios sociales hemos puesto en marcha una oferta pública de empleo de mil catorce plazas

sus profesionales son nuestro principal activo realizamos una gran inversión en nuevas tecnologías

con la tramitación de más de cincuenta millónes de recetas otro hito es el plan de mejora de atención telefónica tanto en cita previa como en atención médica con más de dos millónes de consultas atendidas este año hemos dado un paso decisivo en la transparencia e información al paciente

ofrece a cada paciente acceso a la documentación clínica

crece la atención sanitaria en euskera contamos con más profesionales con perfil lingüístico acreditado avanzamos en la elección del idioma de atención

estamos haciendo una apuesta por la generación de valor y oportunidades económicas y uno de los tres ámbitos de especialización inteligente de euskadi es biociencias salud la estrategia de investigación e innovación sanitaria cuenta con proyectos como biodonostia o biocruces ya acreditado como instituto de investigación sanitaria y cuyas obras ya están en marcha

en este ámbito euskadi realiza un enorme esfuerzo de inversión para la modernización de la red de transporte y movilidad especialmente ferroviaria

en bilbao nos encontramos en la fase final de la línea tres de metro

zurbaran o matiko avanzamos también en el diseño definitiva de la estación del casco viejo en donostia este año se inicia la construcción de la estación de loyola herrera y finaliza el diseño de la conexión de herrera altza que será licitada a finales del próximo año

que entrará en servicio en unos meses en vitoria gasteiz en colaboración con diputación y ayuntamiento apostamos por la movilidad integrada la extensión del tranvía al sur y la incorporación de los barrios de salburua y zabalgana al esquema multimodal

supresión del paso a nivel de mendizur en bedia mejora de la estación de hendaya

hemos conseguido el compromiso de inversión de la unión europea con el tren de alta velocidad y mantenemos el horizonte de dos mil diecinueve comprometido por el gobierno español esta semana hemos encauzado la llegada a las capitales bestetik aireportuen etorkizuna funtsezkoa da

comienzo por la reactivación económica y el empleo el reto es seguir construyendo futuro económico esto es desarrollo humano y crecimiento sostenible un desarrollo que asiente la recuperación económica el empleo de calidad y garantice la solidaridad

este incluso requiere continuar con la modernización del territorio culminar las inversiones en transporte público

educación y universidad seguir avanzando en el desarrollo tecnológico no vamos a dar ni un paso atrás en el estado social de bienestar

de la crisis este nuevo impulso se sustenta en tres prioridades estratégicas innovación empleo y estrategia

es la innovación una economía competitiva y equilibrada se construye sobre la base de la innovación hemos abordado la reordenación

con mayor concertación público privada fortalecido los criterios de evaluación y eficiencia y la aplicación de una estrategia de especialización inteligente

el presente ejercicio hemos aumentado la inversión en innovación tecnológica

que debemos recuperar aún más la inversión y este es el compromiso adquirido por el consejo de ciencia tecnología e innovación la pasada semana

de especialización inteligente y hemos decidido que es el momento de recuperar el impulso para situar a euskadi en el pelotón de cabeza de la innovación en europa somos conscientes de esta necesidad porque estamos sentando las bases

con la fabricación avanzada este año hemos puesto en marcha tres nuevos programas dotados con cinco coma dos millónes

vamos a impulsar la investigación científica y universitaria de excelencia tenemos proyectos de investigación estratégicos relacionados con la energía

en ambientes hostiles hemos firmado un convenio de colaboración para el desarrollo de proveedores locales y el impulso de oportunidades tecnológicas en el ámbito oilgas trabajamos con el sector privado para poner en marcha proyectos con propulsión a gas en el transporte marítimo

corresponde al conjunto de instituciones universidades y centros de investigación de excelencia centros tecnológicos empresas y sociedad el gobierno va a realizar el esfuerzo añadido que le corresponde

que se contemplaba en el plan de ciencia tecnología e innovación para dos mil dieciséis

nuestra prioridad fundamental es el empleo especialmente el empleo juvenil recuperar empleo es nuestro objetivo central

hemos avanzado aunque no es suficiente anuncio que el presupuesto del próximo año va a impulsar los planes de empleo con especial atención al colectivo juvenil

de incrementar un cincuenta por ciento el presupuesto del programa lehen aukera

a través de la incentivación de contratos laborales en prácticas vamos a aumentar también los programas de atención y formación ligados a la contratación de personas desempleadas de larga duración el tercer pilar

el futuro de euskadi depende de nuestra capacidad de tener un espacio y un papel propio en el mundo global es necesaria una visión compartida de euskadi basque country basada en la colaboración público privada las oportunidades están al alcance de nuestra mano

con las capitales vascas cooperando y unidas por el tren de alta velocidad la integración de puertos aeropuertos plataformas logísticas y redes de transporte en una logística y conectividad combinada estrategia vasca contra el cambio climático y a favor de la sostenibilidad apuesta por la tecnología basque industry cuatro punto cero y la agenda digital de euskadi especialización inteligente

adaptación académica al entorno europeo y programas de formación en el extranjero

con la anunciada incorporación de navarra donostia capital cultural europea dos mil dieciséis y proyección de nuestras instituciones culturales

gizartea elkartzea mantengo la convicción personal de que la sociedad espera que contribuyamos cuanto antes y del modo mejor posible

y un principio renovador de la convivencia el extremo

positivo a día de hoy sigue siendo necesario definitivo de eta un final que garantice de forma segura

y su desaparición completa la sociedad vasca exige a eta que se disuelva y exige también el reconocimiento del daño injusto causado algo tan sencillo como decir que matar estuvo mal que atentar contra los derechos humanos de las personas estuvo mal este es

el encuentro social este compromiso implica intervenir con propuestas concretas buscando el consenso en todas las direcciones institucionales y políticas no vamos a permanecer parados vamos a tomar la iniciativa y a asumir riesgos

seguiremos actuando con las políticas públicas de víctimas tal y como adelantamos en los encuentros de los días cuatro y cinco de junio desarrollaremos el compromiso batera para que las políticas de víctimas miren también al futuro

el gobierno vasco seguirá exigiendo a eta un proceso de desarme y desaparición definitivo irreversible incondicional total y verificable

desde principios legales y humanitarios el estado de normalidad penal y penitenciario orientado a la reinserción y la convivencia

sobre la base de los documentos zuzen bidean e hitzeman reclamamos

que levante el veto colectivo que impide a los presos optar a los beneficios penitenciarios individuales

y resocialización seguiremos proponiendo y promoviendo una pedagogía de la autocrítica en derechos humanos como modelo de gestión política y constructiva del pasado la puesta en marcha del instituto de la memoria la convivencia y los derechos humanos

este otoño presentaremos una propuesta para consensuar una ley de reconocimiento a víctimas de vulneraciones de derechos humanos

una vez pasadas las elecciones generales el gobierno vasco preparará la propuesta de un acuerdo base para la convivencia se inspirará en el suelo ético y se presentará como herramienta para crear un espacio compartido en materia de convivencia a medio plazo tenemos un objetivo claro

el encuentro social en tercer lugar abordo el compromiso de sentar las bases para un nuevo estatus político para euskadi

mi compromiso recogido en el programa de gobierno fue

y desde el máximo consenso posible sentasen las bases de su desarrollo futuro la ponencia se constituyó el veintisiete de marzo de dos mil catorce

el debate se produce en la institución que mejor refleja la pluralidad de la ciudadanía

y ha contado con la participación de todos los grupos y hemos sido capaces de escuchar y escucharnos con respeto

defiendo la necesidad de residenciar el debate de futuro en el seno de la ponencia puesto que seguimos mostrando la tendencia a plantear nuestras propuestas e iniciativas fuera de este ámbito el gabinete que presido sí ha puesto a disposición de la ponencia todos los informes que le han sido requeridos

las posiciones manifestadas por los diferentes grupos políticos no ofrecen todavía hoy

ahora bien es evidente que compartimos mayoritariamente el reconocimiento de que las instituciones de las que se dotó nuestra comunidad

asumimos que el estatuto se encuentra incumplido compartimos la singularidad que reconoce el sistema de concierto económico en cuya defensa coincidimos prácticamente casi con unanimidad y sentimos la necesidad de actualizar el autogobierno y adaptarlo a la nueva realidad de la europa

respetuoso con el trabajo de la ponencia creo honestamente

aboca para sí el conocimiento de un asunto tan relevante como la organización de la convivencia futura el gobierno debe centrarse en prestar a la cámara el apoyo que esta le pueda requerir así he obrado durante el

en rigurosa consecuencia con mis convicciones mis convicciones se mantienen de hecho dentro de dos semanas se cumplirá el aniversario del primer gobierno vasco y hacemos nuestra la aspiración del lehendakari aguirre de búsqueda del acuerdo para dar cauce a lo que él dijo el anhelo

mis planteamientos y aspiraciones políticas mis ideas sobre euskadi y su derecho de autogobernarse se sitúan como no podía ser de otra forma en el acervo de la formación política a la que pertenezco duela lau urte konstituzioaren

el futuro del autogobierno vasco pasa por la recuperación del espíritu del pacto el mutuo reconocimiento y la bilateralidad ambicionar un nuevo futuro

en la construcción de esta euskadi el autogobierno ha abierto la puerta a la institucionalización de euskadi su ejercicio nos ha permitido alcanzar

y confianza institucional más elevadas de nuestra historia afirmo que el autogobierno vasco debe evaluarse y reformularse no como un edificio de nueva planta a erigir en el aire

sino desde la realidad de lo construido durante los últimos treinta y cinco años el autogobierno vasco

ampliando los poderes ya reconocidos adaptándose a la realidad europea y ensanchando los límites de la construcción institucional y social

asumida esta realidad tampoco podemos ignorar las deficiencias del desarrollo estatutario que se concretan en la falta de culminación del proceso de transferencias

expresión actualizada de los derechos históricos fue concebido por la sociedad vasca

en estos años se ha producido una degradación de la naturaleza del estatuto estamos sufriendo una degradación práctica de la capacidad y rango jurídico y simbólico del autogobierno vasco provocada por la legislación invasiva y la jurisprudencia que devalúan

el marco actual no respeta el espíritu inspirador del pacto estatutario de mil novecientos setenta y nueve que asentaba los principios de sujeto bilateralidad

los instrumentos que garanticen el desarrollo pleno del estatuto tampoco asegurar las garantías de cumplimiento que preserven el carácter pactado del mismo

tengo que apelar incluso exigir al estado y a los gobiernos del estado recuperar el espíritu y el contenido con el que trabajamos pactamos y la sociedad ratificó el estatuto de gernika

hemos sufrido una mutación del pacto estatutario es necesaria una nueva convención es indispensable reconocer

al autogobierno de euskadi el rango deseado por la ciudadanía vasca la singularidad de euskadi se basa en el engarce jurídico

que ampara y respeta nuestros derechos históricos libertades originales preservadas mediante pacto he sido y sigo siendo partidario de explotar

de que por esta vía podemos avanzar en un mayor autogobierno y desarrollar las políticas económicas sociales y culturales que permitan afrontar con garantías

europa en construcción por esta vía podemos encontrar ámbitos efectivos de coincidencia y confluencia con navarra en la medida

y vocación de autogobierno estoy convencido de que tenemos capacidad de alcanzar un nuevo pacto desde el mutuo reconocimiento y la bilateralidad efectiva creo en la unión desde la voluntad democrática y la libre adhesión no creo en la unidad

y la unilateralidad como nación foral que somos nuestros derechos históricos amparados y respetados

de lograr pactos institucionales adoptar decisiones políticas que sean refrendadas por la ciudadanía y respetadas por esta vía

el cauce para avanzar en el autogobierno alcanzar el reconocimiento como nación y seguir construyendo euskadi en una europa más fuerte y abierta respeto el trabajo de la ponencia y confío en sus resultados nuestro punto de partida como representantes del pueblo vasco es

incluida su disposición adicional tal como fue refrendado por la ciudadanía vasca

representa una exigencia democrática básica

debe pasar por un nuevo refrendo social he compartido con ustedes mi visión y convicción de que el momento demanda compromiso

de aspiraciones políticas y sentimientos de pertenencia nacional que se dan cita en la sociedad vasca legebiltzarkideok señoras y señores

el programa de gobierno asumo el compromiso de completar el programa y cumplir la palabra dada ante la sociedad

no es mi estilo plantear declaraciones de intenciones más o menos difusas

los proyectos en los que trabaja este gobierno y concluyo con un resumen de los principales compromisos que vamos a materializar estos próximos meses

empleo público puertos y transporte marítimo organización y funcionamiento del sector público vasco documentos y archivos transparencia participación ciudadana y buen gobierno y formación profesional

oferta pública de empleo de osakidetza con mil catorce plazas

nuevas plazas oferta pública de educación con doscientos setenta y cinco plazas

además hemos culminado la consolidación de la nueva plantilla estructural de lanbide con novecientos dieciocho plazas lo que supone ciento cuatro nuevos puestos hemos comprometido la oferta pública de empleo de osakidetza para el primer trimestre del dos mil dieciséis

y trabajamos una oferta pública de empleo en educación avanzamos en infraestructuras para la modernización de euskadi nueva oficina judicial de donostia e infraestructura judicial en bilbao destinada a la fiscalía de bizkaia

su inauguración ayer mismo centro de educación de mariturri en vitoria gasteiz

avanzar en la red del metro donostialdea con la entrada en servicio de los tramos herrera altza lugaritz easo nueva estación de loyola

iniciar los trabajos de recuperación de la bahía de pasaia en ejecución del convenio interinstitucional integración portuaria con las plataformas logísticas de jundiz y arasur

abrir los centros de salud de zestoa santutxu miribilla y kanpezu iniciativas

elaborar las nuevas directrices de ordenación territorial diseñadas bajo el modelo de euskal hiria culminar la puesta en marcha

en el mundo complementar y completar la ejecución del sexto plan para

del gobierno gestionar de forma concertada la capital europea de la cultura donostia dos mil dieciséis consolidar el proyecto de fuente de neutrones ess

el gobierno vasco mira al futuro con mayor confianza y esperanza

las dificultades e incertidumbres saben de nuestro compromiso con el rigor económico en las políticas públicas vamos a consolidar lo logrado vamos a seguir garantizando los servicios públicos esenciales la protección social y las políticas de reactivación económica y creación de empleo

y en la buena dirección soy realista consciente de las dificultades y creo en la fuerza y en la capacidad de euskadi de las empresas

la fórmula no va a ser diferente trabajo esfuerzo compartido y colaboración saldremos adelante

gracias a los acuerdos políticos que hemos sabido alcanzar a la concertación público privada y la participación de la sociedad gracias a la estabilidad y a la colaboración gracias al trabajo y al compromiso de todas las personas que se esfuerzan

educación lanbide y el conjunto de la función pública

que mantengamos el espíritu de colaboración sigamos trabajando juntos en las empresas familias colectivos sociales administraciones públicas

soy plenamente consciente de la responsabilidad de integración que nos corresponde el futuro de euskadi es un trabajo colectivo lo que alcancemos